gracias presidenta lehendakari jauna señorías buenas tardes

y justifica su iniciativa trasplantando parte del diagnóstico que realiza sobre soberanía alimentaria en su programa electoral autonómico a esta proposición no de ley

como un sector prioritario porque aporta a nuestra sociedad una serie de intangibles de indudable valor e incorpora elementos no reflejados en el producto interior bruto entre los que podemos enumerar la fijación y la gestión de la población rural

a ser un foco de atracción por su dinamismo económico contribuyendo al mantenimiento de un medio rural vivo

la retención de agua potable la disminución del riesgo de incendio la producción de biomasa vegetal la identidad social de nuestro país con su agro a través del reconocimiento de su actividad en la producción de alimentos tradiciones paisaje

vista esta situación los objetivos desde las administraciones públicas entendemos que deben consistir en lograr un primer sector vasco abierto dinámico competitivo

que conecte realmente con las demandas de los consumidores que contribuya a la sostenibilidad ambiental y al mantenimiento del paisaje que en su mayor parte sea autosuficiente financieramente

que en el momento actual la producción agraria se encuentra en una situación complicada por el mantenimiento en niveles muy bajos de los precios agrarios y la incertidumbre de los mercados que se han convertido además en una constante que afecta a todo el sector

acordes a nuestra situación social y económica y sin entrar a valorar la bondad o los problemas del concepto de soberanía alimentaria nosotros sí creemos necesario explorar nuevas alternativas que hagan posible impulsar un sector que necesita cada vez más de más apoyos y sobre todo de medidas

y si definimos la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados accesibles producidos de forma sostenible y ecológica

nos encontramos con conceptos que pueden ser aplicados en el país vasco dada su holografía y su peculiaridad cultural por eso los socialistas vascos habíamos presentado una enmienda a la totalidad

una enmienda que lo que pretendía realmente era disponer de un documento en el que poder valorar de qué estábamos hablando cuando utilizamos el término de soberanía alimentaria

la potenciación de la visión empresarial del profesional agrario el impulso de la producción de calidad diferenciada la promoción y el impulso de la reconversión de las explotaciones el impulso del acceso de los productos a los mercados más competitivos que hiciese una valoración de los efectos intangibles del primer sector ante la sociedad que promocionase los procesos de mayor valor añadido en fin en el proceso de consenso que hemos llevado a cabo

nacionalistas vascos y ese consenso que ha requerido la enmienda transaccional

dejar clara cuál era nuestra apuesta respecto al sector primario y por ello hemos transado esa enmienda que guarda mucha relación

en coherencia con lo realizado y propuesto en esta cámara hace ya algunas legislaturas porque y creemos necesario recordarlo los socialistas vascos

y alimentaria de euskadi presentamos ya en el año dos mil ocho una enmienda de adición en la que proponíamos incluir en el listado de definiciones de dicha ley

la renta unitaria de trabajo la explotación familiar agraria la unidad de trabajo agrario la seguridad alimentaria la trazabilidad la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria entendíamos que se hacía necesario incluir determinadas definiciones

en el ámbito de las actividades que se desarrollan en el primer sector al objeto sobre todo de clarificar cada uno de esos conceptos y que manejásemos todos el mismo lenguaje al hablar sobre ellos pero aquella enmienda junto con otras tantas casi cercana a setenta y dos enmiendas no fructificó

no fueron ni mucho menos todos y tampoco fue el concepto de soberanía alimentaria el que pudimos introducir en dicha ley pero tampoco andamos muy desencaminados al intentar al menos hacer ese esfuerzo de inclusión en la ley el propio gobierno vasco de aquel entonces en la octavo legislatura promovió la inserción de anuncios oficiales varios en revistas y suplementos en los que se promovía precisamente qué era la soberanía alimentaria

y de su reivindicación global está el impulso de un modelo político social y económico

no compartimos en el ejercicio de sus competencias el país vasco ha venido dotándose de documentos estratégicos con el objetivo fundamentalmente de planificar y ordenar su actividad

que ha ido adquiriendo la acción política sobre el sector primario derivada por una parte de la diversidad de niveles institucionales que están implicados en su gestión y de otro lado del amplio

se han fijado las principales directrices de promoción económicas sectorial

sobre un medio vivo y en el que no todas las funciones son recompensadas por el mercado y sobre la base de que la sociedad vasca debe entender

siempre va a precisar de un necesario y justo nivel de apoyo que compense sus déficits estructurales y de adaptación así como el propio mantenimiento de su actividad si realmente quiere seguir conservando un espacio rural vivo que tanto beneficios le comportan

esta enmienda que nueve párrafos trata como decía antes varios de los principios del propio término y del propio concepto soberanía alimentaria y que creemos que son posibles

un reto al día de hoy de poder afrontarlos con seriedad

decir que vamos a votar en contra de la iniciativa por varios motivos

porque eh bildu ignora el buen hacer de nuestros productores que no campesinos

del medio rural porque eh bildu ignora que los productores del país vasco se han caracterizado

con las mejores técnicas del momento porque eh bildu ignora que nuestros productores son mayoritariamente propietarios de sus explotaciones porque

y nuestra población rural nada tiene que ver con la comunidad

como rezan en sus revistas que nuestro folclore

como ponen de fondo en sus páginas webs porque eh bildu ignora que los mercados locales un referente en nuestros pueblos y comarcas porque ustedes eh bildu ignoran utilizan y manipulan al sector primario como elemento de lucha

porque eh bildu pretende modificar la conciencia social sobre el sector primario en base a falsos mitos a falsas afirmaciones contrastadas o demostradas porque eh bildu ignora que la transformación del mundo rural y el sector primario es fruto de la colaboración de las administraciones de los agentes sectoriales no del capitalismo neoliberal y los mercados

la autarquía alimentaría como proponen desde eh bildu nos llevaría levantar barreras

internacional y bloquear las importaciones y exportaciones esto sí que provocaría más hambre en muchos países y distorsión de los mercados su propuesta sacaría nuestras producciones de los mercados expliquen qué hacemos con la producción de rioja con la producción de cereal

cuando hablamos del sector primario de agroalimentación hablamos de un sector estratégico entendiendo que la alimentación es presente y futuro no pasado

rural es garantizar rendimiento económico en la actividad agraria unido

de los recursos naturales y a niveles de residuos adecuados de manera que se mantenga la diversidad biológica

teniendo como objetivo principal fomentar productos saludables y de alta calidad

la biodiversidad en españa el conjunto de la cadena alimentaria supone el ochenta por ciento de los ingresos

de los productores agrarios la producción total del sector agroalimentario supuso el año pasado ciento treinta mil millónes de euros el número de ocupados

es un sistema extraordinariamente importante muy poderoso pero

está compuesto por empresas grandes y pequeñas pymes y muchos productores individuales

lo que le da una enorme vulnerabilidad tenemos el primer informe de sostenibilidad

con datos comparativos de los últimos treinta años eso que usted pone de referente como historia informe amplísimo

ganadera cada vez consume menos agua y energía pierde menos suelo y emite menos gases a la atmósfera para producir una unidad de producto y la contribución que ha tenido las nuevas tecnologías en estos actos

usted nos hablaba de mercados locales de exigencias a las multinacionales

de seguridad y usted nos propone mercados locales

que es lo que están haciendo haciendo competencia desleal al pequeño comercio de muchos pueblos eso es lo que nos propone señor de eh bildu como le decía todos los agentes

y agroalimentario insisten en aumentar su eficacia y su competitividad además de reducir el desequilibrio de las relaciones entre los distintos operadores de la cadena con el objeto de ordenar clarificar y dotar de seguridad jurídica

el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria proyecto elaborado con gran consenso

proyecto pionero en españa y en europa necesitamos un sistema alimentario que funcione correctamente porque de él depende el ochenta por ciento de la renta de los productores

a alimentos sanos variados en calidad y cantidad el gasto

señor lazarobaster le voy a decir lo que dijo el portavoz de coag sindicato a su ideología hace pocos días en el congreso necesitamos un sector alimentario potente y para ello necesita renovarse continuamente necesita invertir

un sector que no innova que no se renueva es un sector destinado a morir si eliminamos la capacidad de inversión

de innovar ponemos en peligro la supervivencia uno de los puntos de la declaración final de la cumbre mundial sobre seguridad alimentariareconoce que incrementar la productividad agrícola es el medio principal

para la producción alimentaria y para conseguir este objetivo

que den respuesta a las necesidades y prioridades del sector agroalimentario y forestal tener la capacidad de alimentar a toda la población

es un reto importante no podemos permitirnos el lujo de renunciar a ningún tipo de tecnología sostenible

ideológicos la agronomía es una ciencia y como tal no entiende de ideologías si utilizamos tecnologías menos eficientes la merma en la producción la tendremos que compensar con más suelo por lo tanto más impacto medioambiental y menos sostenibilidad señor lazarobaster portavoz de eh bildu

ustedes venden humo felicidad barata e inmediata la épica está de más más que un consumo responsable parece lo que proponen ustedes un consumo hedonista y comodón no hablan de las pésimas condiciones laborales de los campesinos indígenas inmigrantes asalariados ni de los asesinatos de campesinos en honduras y otros países que cuentan

del mismo estado cómo pueden mirar para otro lado ante los gobiernos de turno depositarios y actores de la soberanía cómo hincan la rodilla ante estados

para usted la historia del país vasco y de la agricultura del país vasco se remonta a hace treinta años mire le voy a leer le voy a decir lo que decía el señor eugenio garagarza en el año mil ochocientos cincuenta y nueve

del caserío ya había sido apuntada a mediados del siglo diecinueve por muchos estudiosos del agro vasco la rentabilidad ha sido una constante que busca

porque ustedes han tenido una luz inspiradora especial es una historia que viene de la propia producción y de la propia actividad la explotación

no se valora el trabajo el valor de la hora de trabajo les es suficiente con subsistir dicho de otra manera no hay maximización

transacciones están guiadas por un precio del mercado que iguale el valor o por lo menos el precio de producción eso que usted dice que ha descubierto de repente

por lo tanto tienen una visión tan corta de la actividad agrícola y ganadera

a inducir en error cuando nos hablaba de falta de variedades y de monocultivos en relación al arbolado existente en bizkaia en el año mil ochocientos cuatro

de arbolado solo había dos tipos robles y castaños esa era la variedad que había en mil ochocientos cuatro y hoy se queja usted aquí de que hacemos monocultivo

usted está mirando para otros estados usted no mira a la agricultura a la actividad forestal a la actividad ganadera del pueblo vasco no piensan en el pueblo vasco

en mover las conciencias sociales en base a argumentos fáciles nada más

la declaración de mil novecientos noventa y seis en la cumbre mundial de la alimentación definió la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria

esta es la definición recoge multitud de subconceptos que no voy a desbrozar porque el tiempo es escaso zuen proposamenak elikadura subiranotasunerako

jatorrizko definizioa onartzea dela leo la justificación de su proposición que dice cambio de modelo afirmando que es diferenciar lo que aquí se produce y priorizar su comercialización en el mercado local de manera inmediata

este no lo explica luego habla de proteger el medio ambiente y la biodiversidad

al principio del texto expresa que en los últimos años ha aumentado sobremanera la dependencia del exterior respecto a los alimentos estos mimbres me parecieron escasos y para profundizar en el trasunto me aproximé a su programa electoral

le llaman soberanía alimentaria a su proyecto como alternativa al modelo imperante que según ustedes lo describen es de seguidismo de las políticas comunitarias de agricultura y pesca sin fomentar caseríos impulsando explotaciones industriales intensificadas incluso yo

que hemos trabajado para impulsar el agronegocio al servicio del capital

según ustedes peor no se podía hacer y debemos de tener un sector agrario superespecializado

y con explotaciones de tamaño gigantesco lo que no cuadra

vuelvo a la proposición y aunque de un plan tratan realmente han cogido el todo por las partes y con algunas de estas sí se han quedado

que no les interesan el propio debate de fondo no les cuadra la aplicación de la totalidad de la propuesta soberana porque una vez más pretenden confundir la realidad de euskadi en europa y la trasponen a la problemática de guinea de honduras de nicaragua

tienen una agricultura que supone bastante más del cincuenta por ciento de su pib asumen su pertenencia a europa y aunque piensan tener una actitud crítica con sus políticas

denunciado por países terceros en la propia definición de soberanía alimentaria recuerdo

en que tuve la oportunidad de estar en una mesa redonda con el líder francés josé bové máximo defensor de la soberania alimentaria y con la directora de la oficina en washington de intermón oxfam organismo que es defensor de la misma filosofía

observando el discurso soberano alimentarista de bové que dijo

es falso afirmar que la exportación puede tener efectos positivos para el campesinado del sur

se trata de algo que no es real la mayoría de los campesinos europeos quieren producir para su mercado local porque es el mercado local el que les permitirá obtener ingresos

y con esto no quiero denigrar la importancia de la agricultura para europa únicamente digo que este asunto es completamente distinto cuando se habla de los países en desarrollo esas regiones en los que la gente no puede hallar otros puestos de trabajo alternativos

para poder alimentar a sus familias y ganarse la vida pues lógicamente entendió como todos los presentes que el modelo propuesto de soberanía significaba exclusivamente

a todo tipo de productos agrícolas y alimentarios lo que dejaba sin posibilidad de expansión comercial

que también pugna por su modelo de soberanía alimentaria modelo que según ellos les permitiría vender en mercados internacionales solidarios

al poco de haber nacido a ser manipulado envejecido y sometido a vaivenes demagógicos

y cubierto con una pátina de ideología la idea de retomar con tonos progresistas el viejo modelo de autarquía que bien podría denominarse y aquí le pega perfecto yo me lo como el subconsciente les ha traicionado

que en las últimas décadas ha aumentado sobremanera la dependencia exterior respecto a los alimentos no dice que ha descendido la producción o el número de explotaciones

no hablan del poco suelo agrario del que disponemos de que somos un país evidentemente industrial

no hablan de agricultura como sector económico solo hablan de dependencia que por cierto

en el fondo la clave de su propuesta de soberanía alimentaria se asienta en los mismos principios que defendió en bilbo josé bové

y acogernos a una moderna autarquía alimentaria sugieren idílicos modelos de sociedad agraria autoorganizada pero con sus criterios

una sencilla manera de potenciar una economía es obligar a consumir lo que en ella se produce se cumple un principio de la soberanía que es

remunerado y otro principio que es que el consumidor puede elegir lo que quiera consumir en este caso sería por ejemplo entre puerros de zeanuri o puerros de abaltzisketa si fuese txakoli hasta tres tenemos o sea que

gama de elección topo de nuevo con su proposición y pone

y esto qué es y voy de nuevo a su programa y leo un giro bolivariano que dice que una de las misiones del que podía haber sido departamento de soberanía alimentaria

fijar el volumen de producción máximo por cada activo y caserío para que la actividad sirva para crear puestos de trabajo

acojona perdonen la expresión pero es lo único que se me ocurre para decir lo que siento

tengo amigos baserritarras con huertas que van a empezar a esconder patatas y zanahorias no se hayan pasado de la cuota que se les haya asignado por cierto seguramente no importa que les llamen campesinos pero como les llamen activos

nuestra realidad agraria es que la pequeña explotación es nuestra marca

estamos hablando de explotaciones agrarias de autoconsumo solo un veinte por ciento de todas son explotaciones profesionales

todas están en manos privadas pero no de multinacionales de baserritarras

negar el derecho de nuestro pueblo a decidir su política agraria alimentaria

cómo no vamos a apostar a que los consumidores elijan lo que quieren consumir solo faltaría adibidez eaj jaurlaritzan zegoenean

hemos trabajado mucho en ellos con aceptación crítica desde el año mil novecientos ochenta y seis con decisiones que no nos gusta

como rejuvenecer a la agricultura política de suelos que ayude a no perder el agrario la agricultura ecológica el apoyo a la agricultura familiar

pero esto no es apostar por la soberanía alimentaria es apostar por un sector agrario adherido a su realidad apegado a su entorno asumiendo sus posibilidades comerciales

son generadoras de valor añadido y estructuradoras de subsectores agrarios en riesgo de desaparición también nos encontraran en incentivar mayores producciones

pero asumiendo nuestra realidad productiva y la necesidad de abrir nuestros mercados para que los consumidores vascos puedan de verdad elegir lo que consumen porque nosotros asumimos de verdad

en definitiva que en la teoría general resultara difícil ponernos de acuerdo

pero creo que hay muchos aspectos en los que no deberían haber problemas de actuar conjuntamente como así lo hemos hecho el resto de grupos en la transacción realizada para terminar

al final de la definición de soberanía alimentaria se cita la expresión sin dumping frente a países terceros intermon oxfam señala contundentemente que el mayor dumping lo efectúan estado unidos y europa con sus fabulosas en sus palabras

miren las teorías políticas o sociopolíticas requieren de la adhesión de las mismas y no a partes de las mismas

en conclusión piensan en el todo para terminal proponiendo solo partes nosotros asumimos muchas de las partes ahí

vascos trabajamos en una visión de la realidad muy distinta a la que eh

porque hoy no resulta posible establecer un plan integral de soberanía alimentaria en euskadi porque no estamos en el punto cero de la creación de la sociedad en la que vivimos el modelo indudablemente podrá ir cambiando podremos mejorarlo pero no podemos cerrar los ojos ante la evidencia que resulta

pero ello no significa que desde las políticas públicas no se trabaje en la defensa del sector primario como un sector estratégico a nuestro modo de ver y por eso hemos intenta introducirlo en la enmienda de transacción es importante hacer referencia a lo que llamábamos el concepto de preferencia comunitaria

la producción propia frente a los terceros países este principio

según el tratado de roma y funcionó durante muchísimos años hasta que las numerosas reformas de la pac y de sus diferentes ocms

una persona sospechosa de izquierdista o de promover el intervencionismo público en la economía

comunitaria los socialistas vascos creemos necesario abrir nuevas líneas de trabajo pero para ello es necesaria no postularse en posiciones absolutamente extremas como en este caso

que no hay posición intermedia posible donde entrar al juego del consenso y eso indudablemente dificulta el ir recolocándose en la política o el ir avanzando

de acuerdo con en el término absoluto de soberanía alimentaria sí tiene una serie de principios que se han estado aplicando

y en esa dirección la soberanía alimentaria constituye una verdadera clave eso lo ponen ustedes en su programa electoral autonómico y me preguntaba usted dónde esta la diferencia ahí está la diferencia por eso nosotros no podemos apoyarles a ustedes en el concepto de soberanía alimentaria claro ustedes lo plantean como una de las claves para

por lo tanto decirle que los socialistas vascos sabemos que el mundo globalizado tiene también efectos perniciosos y que en la soberanía alimentaria se trata

de la agricultura la introducción de tecnologías sostenibles en favor de la productividad el establecimiento de mecanismos de control de calidad aspectos de este concepto de soberanía alimentaria con los que

pero no podemos ser tampoco ajenos a la globalización propiamente a las políticas públicas que se están llevando a cabo a nivel internacional nacional o autonómico y que deben velar y en esas estamos haciendo políticas por el mantenimiento de un sector primario

y podrán modularse algunos efectos perniciosos que efectivamente pueda tener la globalización pero no podemos ponernos un vendaje y decir que no existe porque realmente existe y esta es nuestra realidad del día a día nosotros hicimos y mantenemos una serie de apuestas por trabajar con el sector

de los recursos naturales y por la preservación ecológica de nuestro entorno rural y apoyaremos cuantos pasos pretendan darse para que

de la sociedad vasca que pide consumir efectivamente productos de la tierra pero sin utopías señor lazarobaster con rigor y mirando al futuro sin añoranzas ni folclores

en una coyuntura por la que está atravesando el sector primario vasco francamente difícil casi nos vienen a decir hoy que cualquier tiempo pasado casi fue mejor

para nosotros los socialistas la opción no es seguir como hasta ahora es decir no hay opciones claro que hay opciones pero no nos podemos poner en posturas absolutamente maximalistas

ahora igual queda bien ante su propio grupo los socialistas no vamos a jugar a eso y por lo tanto el modelo

entendemos que no es el modelo de futuro para el sector primario y sí el ir haciendo las cosas mejorándolas día a día con propuestas sensatas y que puedan ser
acordadas por mayoría muchas gracias eskerrik asko corcuera andereak

menosprecio no nada más que no le puedo creer

y no le puedo creer porque usted se contradice permanentemente si solo podemos producir esa cuota que ustedes nos quieren imponer como autoconsumo pues aumentaremos el hambre en el mundo cómo va a paliar usted el hambre que hay en el mundo si no aumentamos la producción

cuál es su teoría para paliar el hambre en el mundo cuál es su teoría

son contradictorios porque ponen en duda y critican la política agraria común pero no conozco a ningún productor agrícola ganadero forestal

de eh bildu que haya renunciado a las ayudas de las pac porque en teoría

si no comparte esas políticas no he visto a nadie que haya renunciado

día internacional de la lucha campesina y decía paremos los acaparamientos de tierras y tiene usted razón o tiene la página web cierta razón yo conozco algunos depredadores

muchos de ellos o algunos de ellos están en sus listas a este parlamento

encontrará este modelo por lo tanto cómo les vamos a creer

no lo ejercen si sus militantes y sus simpatizantes del sector primario

los mayores productores en muchas zonas del país vasco pero cómo les vamos a creer no veo a nadie que produzca agricultura o ganadería en los términos que usted propone aquí a nadie usted nos propone que hagamos

ganadero y eso es otra cosa una cosa es la actividad agrícola ganadera forestal y otra cosa es

a hacer determinadas actividades en la huerta en el campo eso es otra cosa pero usted lo que propone aquí no genera actividad económica no genera desarrollo en el ámbito rural eso no es un modelo ni ustedes mismos lo siguen por lo tanto no les puedo creer porque no lo aplican

rápida fácil barata para limpiar las conciencias para tener seguidísimo para

calan bien nada más o sea usted no viene aquí a defender al sector primario viene a dar publicidad

de muchos de los productores ni con lo que es la actividad agrícola ganadera y forestal por lo tanto de verdad

porque es que no tiene ningún sentido se agota por sí misma nada más muchas gracias eskerrik asko

la resolución lo cual no quiere decir que compartamos toda la teoría que

pero si sé no sé por qué se sorprende que sepa es decir por ejemplo yo me considero un hombre muy ilustrado en anarquía

no lo he aplicado nunca quiero decir es más para usted soy de derechas

el ser experto o conocer de las cosas no significa que nos las apliquemos pero yo estudio los temas que hay que trabajar los estudio

aquello me ilustro por solo por osmosis de la presencia

y luego habla de distintos sistemas de regulación de mercado pero ha ido cambiando las políticas europeas

luego son las cuotas luego serán otros sistemas y por qué no podemos compartir por qué odia tanto la agroindustria la agroindustria es un gran regulador es un gran regulador

si usted lee los programas electorales nuestros verá siempre el apoyo a la agricultura familiar

la venta de proximidad también y la agroindustria también por ejemplo los mejores patateros los patateros alaveses que más garantizado tiene el precio sabes cuáles son

los otros que no tienen esos contratos están dependiendo del precio de la patata en polonia saben hacer patatas pero no saben el precio que va a tener mientras que el que tiene un contrato con una industria trasformadora sabe el precio que va a tener

y tiene que estar en grandes macroindustrias no pero es una posibilidad también comparto con usted lo de ya lo hemos hablado más de una vez de lo reformar la ley de sanidad

es decir lo que hemos hecho nosotros es sacar el concepto de soberanía alimentaria y desgranar aspectos en los que nos podemos poner de acuerdo

porque nosotros defendemos un país en el que la agricultura sea un sector estratégico considerando todas sus visiones estructuradoras del territorio las medioambientales las sociales y económicas

estructurar una agricultura viva en un territorio comercial complejo y cada vez más abierto tiene una ventaja poder vender fuera y una desventaja

lo que no aceptaremos es cerrar nuestras fronteras para de una manera artificiosa recrear un sector que para darnos alimento a todos requeriría cambiar nuestro propio paradigma económico y ahí amigo tenemos problemas

ustedes que propusieron en su programa electoral incluso presentaron a la que iba a ser consejera de soberanía alimentaria del gobierno vasco por qué

innovación desarrollo rural y turismo qué hace el turismo con la alimentación soberana por cierto departamento que el pasado mes de julio

es soberanía sacar productos de nuestros mercados para mejor competir no lo sé también parece que la agricultura soberana es promover en todos los pueblos de gipuzkoa las huertas de ocio están muy bien

pero no se dan cuenta que cada una de esas huertas genera producciones excedentarias

todo lo que le sobra esas ventas esos regalos sacan compras del mercado

qué imaginaría el gremio de fontaneros si un ayuntamiento ante una lonja que tiene libre crea talleres de ocio para aprender fontanería seguramente montarían un lío tampoco han aclarado

mientras que la definición del concepto acepta como ya he dicho a pueblos

para el soberanismo vuelvo a repetir aquella frase que ponen en su programa

de fijar el volumen de producción máximo por cada activo y caserío para que la actividad sirva para crear puestos y no para apoderarse del mercado

de otros sitios porque utilizan dos veces activo y dos veces en vez de caserío hacienda de dónde habrán sacado ese programa han conseguido hasta contradecir al mismísimo lincoln que dijo que la demagogia es vestir ideas menores con palabras mayores

con semántica de la pequeñita en conclusión se aferran a la original idea de la soberanía alimentaria como nuevo paradigma concreto de su abstracto proyecto global para terminar por someter a todo el país a un nuevo trágala como su teoría de las basuras

zurea da hitza buenas tardes gracias señora presidenta
lehendakari señoras y señores parlamentarios bien

cuatro grupos en relación con esta cuestión y yo creo que seré bastante breve una imagen bengalas

violencia en las gradas del estadio de anoeta el veintinueve de diciembre pasado en la celebración del partido amistoso entre las selecciones de euskadi y de bolivia unos cientos de

catorce heridos entre estos a los que manifestamos desde aquí una vez más nuestra solidaridad y a resultas de todo ello pues cerca de veinte expedientes policiales imputados

una violencia inusitada que no se podía prever decía la consejera bueno puede ser discutible pero ahí está esa valoración una violencia inusitada

prever y perfectamente organizada por los de siempre es decir la forma habitual en la que se emplean las juventudes

y todo ese mundo que incluso llega a utilizar el deporte lo cual les da igual la práctica

propagandísticos para sus fines violentos para sus fines de ruptura los detalles de lo acontecido ya los ofreció en esta cámara

imágenes para la historia ya fueron recogidas por fotógrafos por televisiones para mayor deterioro de nuestra imagen

informe policial y del análisis de la actuación de los responsables de orden público la propia consejera reconoció

errores el hecho es que hay que calificar en este parlamento lo sucedido tratar sobre todo de que no se vuelva a producir y desde luego algunas conclusiones del análisis de esta cuestión y sobre todo de la aprobación del texto

la actuación policial efectivamente ya fue calificada estudiada por los distintos grupos parlamentarios en la comisión de seguridad pasada en febrero

porque se pongan los medios para que esto no se vuelva a producir para que ningún grupo radical vuelva a lesionar nuestros intereses deportivos y nuestra imagen de país el campo de fútbol de anoeta y el partido amistoso entre las selecciones

en escenario en excusa respectivamente de unas expresiones de valores y de conductas a los que nunca debe estar vinculado

por sí mismo y todo todo el hilo conductor de la radicalidad violenta fue una vez más la izquierda abertzale pero qué ejemplo fue todo eso

en anoeta ese día qué ejemplo para los menores para los niños para los jóvenes qué imagen se traslada con esa expresión violenta del país vasco al exterior

además en relación con la actividad deportiva por qué esta utilización de un encuentro amistoso

repugnantes socialmente e inaceptables deportivamente por supuesto el departamento de seguridad pero el departamento de educación

y trabajar con el resto de autoridades para que este tipo de incidentes no se vuelvan a producir en ningún espectáculo deportivo y por ello hay que poner a trabajar también al comité contra la violencia en el deporte que está perfectamente regulado y tiene unas funciones que luego recordaré

establecido para el partido y fijándonos sobre todo en las consecuencias de las acciones violentas es decir catorce

riesgo un gravísimo riesgo que corrieron miles de personas por el lanzamiento de material pirotécnico de objetos contundentes por parte de ese grupo de radicales violentos es necesario consideramos así que el parlamento vasco declare su total rechazo ante estos hechos y hemos firmado con el grupo socialista

con el grupo nacionalista y nosotros mismos una enmienda de transacción que dice lo siguiente y que es clara el primer punto es el parlamento vasco condena los hechos lamentables ocurridos en el partido entre las elecciones de euskadi y bolivia que causaron

en el mundo eso está claro una vez más tenemos que condenar unos lamentables hechos protagonizados por los de siempre el segundo punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en cumplimiento de la normativa vigente

para evitar que los errores en el dispositivo de seguridad vuelvan a repetirse bueno ya hemos hecho el planteamiento de lo analizado este parlamento ya lo ha hecho en la comisión de seguridad de febrero se reconocieron por parte del departamento algunos errores

para que esos errores no vuelvan a repetirse pero en cualquier caso yo creo que es bueno que el parlamento vasco

a las autoridades desde luego que esos errores no

la integridad física de por supuesto los policías pero también de todos los asistentes a esos actos masivos estén perfectamente salvaguardados y como tercer punto nosotros sí que

se analice más allá de lo que sean las medidas prácticas puntuales de un departamento de seguridad de la policía o de la organización puramente del espectáculo

a que una vez renueve los miembros del comité vasco contra la violencia en el deporte y realice su primera convocatoria trate entre otros el tema de los incidentes de anoeta

el comité vasco contra la violencia en el deporte tiene una serie

en su decreto regulador en relación con realizar

de la violencia en el deporte aprobar programas de prevención de la violencia en el deporte y promover acciones concretas

entidades organizadoras de competiciones deportivas y desde luego el establecer una serie de cuestiones sobre estas circunstancias sobre la violencia en el deporte lógicamente

como para que recoja un informe concreto este comité que por eso mismo tenemos que decir

y que analice está claro que la composición del comité es la que es y lo preside la consejera de cultura en este caso el área donde está adscrita la consejera de educación política lingüística y cultura el área donde está adscrita deportes

se tiene que analizar esta circunstancia nosotros hacíamos una pregunta también a la consejera en relación con si piensa reforzar sus funciones

kiroalde si piensa reforzar sus funciones tras lo acontecido en diciembre de dos mil doce en el estadio de anoeta

dice que trabajará y se centrará básicamente lo dice la propia consejera en los programas de prevención fundamentados en los datos recogidos así como los estudios realizados en relación con esta cuestión

para demostrar que se ha trabajado en serio en relación con esta cuestión ya sabemos

de algunos acontecimientos deportivos lamentablemente por parte de los de siempre por parte

esperemos que el año que viene no ocurra esto que se tomen las medidas oportunas y desde luego agradezco

y sobre todo el hecho de que el parlamento pueda condenar estos

de debatir con algunos responsables sindicales de la ertzaintza

por actuaciones injustificadas desproporcionadas en un momento además en el que arrecian críticas por el caso cabacas nafarrate o por hechos producidos en el askegunea en donosti ante una movilización ciudadana pacífica

a esta visión trayendo aquí otro ejemplo de actuación policial también peligrosa

desproporcionada en la comparecencia que se celebró en la comisión de instituciones justicia y seguridad la propia consejera dejó más dudas que

en su relato de los hechos beltrán de heredia no pudo establecer

relato comprensible de los hechos vividos en anoeta

para obtener objetos arrojadizos objetos arrojadizos para arrojarlos a quién

lamentables se produjeron una vez se había personado la ertzaintza los vídeos que hemos podido visualizar así lo indican

la actuación violenta de algunos pocos aficionados y el pánico de todos los demás

produjeron una situación irrespirable insoportable a la que no quito ni un milímetro de importancia sin duda las bengalas obligaron

pero no es cierto que estas pusieran en riesgo la vida y la integridad de cientos y miles de personas como se ha venido a decir eso no se produjo

cargas en la propia grada entonces se generaron

de las bengalas o de las cargas policiales que se sucedieron beltrán de heredia llegó a decir en su comparecencia que

en el momento que cesa la carga policial y se repliegan remiten los incidentes más claro no se puede decir aktuazio horrekin

sí muchas gracias presidenta buenas tardes a todos efectivamente lo

con motivo del partido de fútbol euskadi bolivia no es una cuestión menor porque efectivamente hoy podríamos tener encima de la mesa

mucho mayores de las que se produjeron en aquella ocasión a nuestro juicio se juntaron básicamente dos cuestiones que

en la comparecencia de la consejera de seguridad en primer lugar la predisposición violenta y provocadora de una serie de aficionados de la izquierda abertzale dispuesta a provocar incidentes

minoritario pero radical y muy violento que aprovechando un partido de fútbol trató de montar escándalo y bronca como en otras ocasiones

en la comparecencia de la consejera de seguridad un despliegue policial a todas luces insuficiente y mal planificado

en criterios partidistas que de seguridad ya que tenían el objetivo de trasladar a la sociedad la idea mal entendida de una nueva policía del pueblo y para el pueblo esta actuación y planificación erróneas no tienen ni excusa ni justificación puesto que los incidentes provocados por esa minoría violenta

eran claramente previsibles al fin y al cabo estábamos hablando de un partido de fútbol de alto riesgo

y a las explicaciones que dio la propia consejera sobre este tema en sede parlamentaria y a lo trasmitido por los sindicatos e incluso por lo trasmitido también por diferentes ertzainas a titulo individual

poco profesional rayando incluso lo irresponsable y que situó

en un entorno de hostilidad manifiesta y de violencia salvaje que ocasionó numerosos daños personales que realmente podrían haber sido evitados

y la suerte por cierto también la suerte evitaron males mayores

es obvio que la responsabilidad de los hechos ocurridos la responsabilidad de estas acciones violentas es de los energúmenos y los cafres

que los buscaron y los provocaron esto queremos por supuesto resaltar la responsabilidad es de ese grupúsculo de personas violentas que fueron a ver un partido de fútbol pero que además de ver el partido de fútbol fueron sobre todo a provocar incidentes

y a provocar a la ertzaintza por lo tanto

que tiene básicamente dos objetivos por un lado que este parlamento condene esas acciones violentas esos hechos lamentables y por otro lado una

corrija los errores cometidos en aquella ocasión para que de esa forma no puedan volver a suceder en el futuro

todos los grupos que criticaron la actuación violenta de esos

nos uniremos para condenar esas acciones y tratar de instar al gobierno vasco para que tome las medidas necesarias

no vuelvan a suceder nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

por desgracia aprovechar la celebración de eventos deportivos especialmente el fútbol

e intolerantes con los contrarios son hechos que se vienen repitiendo desde hace tiempo y con demasiada frecuencia

el consejo de europa impulsó el convenio internacional sobre la violencia seguridad e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas

por españa el convenio propuesto pretendía desarrollar acciones preventivas en esta materia en el estado español

y sus correspondientes decretos de desarrollo en marco jurídico contra la violencia el racismo la xenofobia y la tolerancia en el deporte en euskadi la ley

en su capítulo décimo también trata de aportar para hacer desaparecer la violencia

en euskadi solemos asistir a un tipo de violencia organizada pertrechada con contundentes elementos para agredir que no se puede relacionar directamente con actitudes

en euskadi la violencia que se desencadena en eventos como el partido celebrado el veintinueve de diciembre pasado entre la selección

está mas relacionada con otro tipo de intransigencia se trata de una violencia enraizada en lo más hondo de un sector minoritario de la población de este país

desencadenada contra la propia sociedad vasca como otras cosas en este país tiene carácter propio tenemos

es la violencia que practican quienes siguen considerándola una herramienta valida para la consecución de cualquier objetivo sea este político social o deportivo es la violencia

en nombre del movimiento de liberación nacional una violencia que se ha pretendido que afectará a todos los que no apoyaban sus objetivos totalitarios no criminalizamos la reivindicación que se podía haber celebrado

el de la violencia que se produjó y condenamos el hecho en sí que se desató en el partido euskadi bolivia estaba prevista y organizada no fue provocada por reacción algún elemento coincidente con la celebración de un partido de fútbol

tenían como objetivo hacer daño al resto de los asistentes al evento a la sociedad vasca en general y particularmente

que debieron actuar para reprimir su acción violenta y que esta no provocara daños irreparables

que podía incluso ese componente reivindicativa pero para los violentos

sin el enfrentamiento los organizadores de aquellos actos y quienes les defienden como usted

en esta cámara pretenden trasladar la responsabilidad de lo acontecido

creo que nada más pretendido denunciar aquí los hechos pero lo ha hecho de una manera

que es mejor dejarles hacer usted ha hecho un relato rosa de equiparación de violencias al final usted lo que pretende es que una violencia

estaban organizados se habían pertrechado de elementos de agresión y esto es algo que se ha constatado clarísimamente para ustedes

para preservar el orden público para asegurar la integridad de la ciudadanía está generando un problema para ustedes que no han transitado todavía el camino a la democracia

nosotros pensamos que la organización del operativo dispuesto para el evento y en las actuaciones concretas se cometieron errores claros algunos de ellos reconocidos por la propia consejera por eso instamos al gobierno vasco

para que en próximas ocasiones no vuelvan a ocurrir queremos llamar la atención del gobierno

y sobre otros de iguales características violentas que han ocurrido en los últimos días en todos los casos el objetivo de los violentos ha sido la sociedad vasca y en concreto la ertzaintza está claro que las actitudes violentas

por ello consideramos imprescindible que el gobierno vasco y el departamento de seguridad mantengan la política de tolerancia cero contra los violentos en estos momentos no se puede bajar la guardia ni permitir que los violentos recuperen espacios de impunidad los socialistas vascos queremos aprovechar también una vez más este debate para mostrar

que componen la ertzaintza igual que la violencia en el partido de fútbol euskadi bolivia los cócteles y piedras encontrados en legazpi en los últimos días iban dirigidos contra nuestra policía

hemos firmado una enmienda de transacción entre todos los grupos de esta cámara

fíjese usted la soledad su soledad en esta materia en la materia de democracia en la materia de los derechos fundamentales de las personas

cuando se discute sobre democracia cuando se discute en contra de la violencia ustedes en esta cámara se quedan solos cuando se antepone la violencia a la democracia a la participación democrática de

ustedes están solos porque no han transitado su camino el necesario camino que tienen que transitar

ustedes están solos y seguirán estando solos hasta que no transiten este camino

que la actuación de la policía vasca la policía democrática la policía civil de este país actúa en función de los poderes que le da el estado de derecho el de preservar la integridad de la ciudadanía
por encima de los violentos nada más muchas gracias eskerrik asko

hobetu nahian lanean ari dela gertakari hauek errepika ez daitezen por otro lado entendemos que la violencia en el deporte no hay que contextualizarla en casos aislados como el que estamos debatiendo

al hilo de esta reflexión hay estudios y datos que deberíamos tener en cuenta y analizar

y actitudes de los diferentes agentes que participan en eventos deportivos estos datos nos arrojan cifras como estas fuera del ámbito escolar

algún hecho violento si nos referimos al deporte escolar los datos son más abultados llegan al diez coma ochenta y ocho por ciento y de estos casi la mitad se producen en categoría infantil eskola kirolari

que el deporte sea parte de la formación integral de nuestros jóvenes y su práctica esté sustentada en valores positivos y en los que prime el respeto y las buenas formas

kirolean dagoen biolentzia saihesteko estas son algunas de las posibles soluciones educación en valores el treinta por ciento

programas específicos para los propios deportistas el trece por ciento aumentar las sanciones para este tipo de comportamiento el once por ciento beraz

convoque rápidamente el comité de violencia en el deporte y que analice también que analice también

y atribuirle esa violencia a los agentes de seguridad a la policía a la federación a los taquilleros pero no directamente a los borrokas yo agradezco al señor maneiro agradezco al señor unzalu señor iparragirre su posición y el poder compartir el análisis con ellos

en el deporte también de ello hemos hablado en este parlamento vasco muchas veces sobre todo a raíz de una interesante resolución que presentó

y sobre lo que nos hemos preocupado últimamente también hemos preguntado al departamento sobre esa cuestión que entronca perfectamente con estas cuestiones sobre todo en el ejemplo espectáculos dan a los menores dan a los jóvenes en relación con la violencia porque quizá una de las

esa vinculación de la violencia en el deporte que no se puede soportar hay que identificar a los responsables señor

la violenta la que usted conoce gritos en favor de eta simbología abertzale estética abertzale eso fue

el desencadenante de la violencia el veintinueve en anoeta eso es objetivo esto está ahí eso está en los atestados eso lo conoce todo el mundo

es ir al fútbol a ver el partido pero para ellos no lo normal para ellos que usted conoce bien para ellos lo normal es ir a hacer daño mire señor arzuaga la policía no provocó a nadie

actuó como pudo y supo no causó daños la policía los únicos responsables son los batasunos los de siempre

no llame aficionados a los que provocaron los incidentes son simplemente delincuentes eso son no son aficionados son delincuentes y usted los conoce bien

usted vive en el mismo mundo de radicalidad que los que provocaron los incidentes violentos y lo sabemos y los defiende

y dale con la aparición de la ertzaintza lo ha repetido un montón de veces la aparición de la ertzaintza fue lo que provocó como desencadenante por mucho que lo repita señor arzuaga ya le oímos en comisión se lo oímos aquí por mucho

quién puso en riesgo la seguridad en ese partido los violentos única y exclusivamente los violentos con su actitud violenta con la pirotecnia

todo el rato constantemente el runrún de la presencia

nuevo ya se lo hemos oído a otros compañeros suyos en este parlamento anteriormente

lo tiene usted muy fácil señor arzuaga si quiere ser creíble es decir si no nos va a repetir otra vez lo mismo

condene usted cualquier ataque que se produzca en cualquier lugar y en cualquier momento ahora antes en el pasado contra la policía autónoma vasca y entonces tendrá credibilidad de momento

permanente en relación con esta cuestión que ya se lo hemos oído muchos veces

el de siempre una vez más tratar de equiparar los ataques batasunos los ataques de los violentos con la actuación de la ertzaintza eso también está en su libro de actuación eso ya lo conocemos es decir que tampoco es nada nuevo es lo que ustedes el discurso que usted ha hecho aquí hoy el discurso que

los ataques de los radicales en aquel partido con la irrupción y con la intervención de la ertzaintza está bien claro que ustedes en ese discurso no nos engañan es decir una vez más en relación con esta cuestión usted señor arzuaga está instalado en ese relato

surrealista de la equiparación de las violencias ya está bien no es creíble

andrea no criminalizamos una reivindicación me decía el señor

un hecho que no compartimos un hecho que consideramos absolutamente

lo he dicho anteriormente lo repito ahora sin embargo me temo que son precisamente ustedes los que quieren dar a ese hecho injustificable

un criterio político son ustedes los que se empeñan en hacer una conexión entre hechos que no tienen ninguna virtualidad política

que si precisamente está haciendo algo es dar pasos dar pasos para evitar que esos hechos se reproduzcan

para poder así utilizar esos hechos como arma arrojadiza

eh bildu no es el camino otra cosa es que tengamos que

de las actuaciones que realiza la ertzaintza y no lo hacemos y no lo hacemos la palabra para criticarlas cuando consideramos y son varias veces cuando consideramos que debemos hacerlo en su enmienda transaccional hablan de catorce ertzainas heridos mientras que para el resto

peligro pues no no es cierto no había solo peligro porque también había personas aficionados heridas y no precisamente por aquellas personas que estaban con bengalas o lanzando petardos sino precisamente por la actuación porque nuevamente tenemos encima de la mesa una dicotomía al entender cómo se debe de enfrentar una situación como la presente por medio de la prevención adoptando las medidas necesarias para evitar hechos mejorando en el momento de la detección

o si pasar al ataque con todo el abanico de pertrechos al alcance con el material y munición más agresivo y letal posible

entrar con todo no sé si esta es la orden que se dio en anoeta pero nos dan

si una vez generado el problema de las bengalas nos preguntamos si no vale más la intermediación para deponer esa actitud o perder el control de la situación

a mucho más de llevarse a la práctica las recetas que algunos aquí hoy

fuera de lugar y cuando según testigos el problema

señor barrio porque consideramos que había distintas responsabilidades en lo que sucedió en la grada de anoeta

me habla usted de credibilidad me da la sensación de que usted se cree en una posición de superioridad ética

que es absolutamente diferente del relato que compartimos el resto de miembros de esta cámara usted ha hecho el relato

para llegar a esa equiparación de una violencia contra otra violencia eso es lo que usted nos quiere llevar y en este caso también lo ha pretendido pero insisto en lo que le e dicho en mi primera intervención ahí se quedan ustedes solos ustedes solos

los demás hemos tenido que sufrir la violencia y sabemos lo que es aguantar aguantar la presión y la violencia por lo tanto ese relato que usted dice que simplemente viene a ser

de que una violencia se provoca porque hay otra violencia anterior y esto no es cierto en ese campo de fútbol en anoeta el veintinueve de diciembre de dos mil doce preparada para crear violencia

igual que yo cómo por las ventanas se subían piedras se subían bengalas se subían petardos

por lo tanto insisto en lo que he dicho antes estaba organizado sabían ustedes

y usted dice que ustedes son los que están dando pasos diga

sí sabía sí había gente en la organización que sabía que iba a ocurrir había gente que sabía que iba a ocurrir esos hechos

vamos a ver usted señor arzuaga dice que están dando pasos para eliminar

estos actos yo mire le voy a dar el valor de la duda ustedes han hecho un paso efectivamente

un uso utilitario de la democracia presentarse a unas elecciones tal y como el derecho exige y han dado ese paso un uso utilitario de la democracia lo cual no quiere decir

hayan transitado a tener una plenitud democrática no han transitado a tener el convencimiento de que estado de derecho hay que respetarlo no han transitado a decir a considerar que las leyes hay que respetarlas que se pueden cambiar pero antes de cambiarlas hay que respetarlas y por eso es por lo que yo le digo que les queda mucho camino por recorrer y si ustedes que se sientan en esta bancada que han hecho ese uso utilitario de la democracia han hecho ese tránsito

y que ustedes han jaleado durante muchos años todavía les queda muchísimo más por recorrer y la primera cuestión es

el primer paso que tienen que dar es no responder violentamente en actos

es no responder violentamente como el otro día en legazpi querían responder violentamente

eso es lo que ustedes tienen que transitar y hacer que toda la gente que a ustedes les ha apoyado

democratizarse todos y democratizar también a estas personas que siguen cometiendo actos de violencia no vale con decir como usted ha dicho aquí

intervino no ustedes tienen que condenar los hechos sin paliativos condenar los hechos no como lo ha hecho usted aquí comparándolo con otra violencia con la supuesta violencia según ustedes que utilizó la ertzaintza sino condenar la violencia desencadenada

de esa democracia cuando ustedes condenen eso lo mismo que condenen los asesinatos de eta

credibilidad también en este asunto mientras tanto le digo lo de antes tendrán ustedes que transitar un camino